lloró al escoger el emplazamiento de su factoría en unas marismas a la orilla de la ría porque sabía que esa fábrica iba a suponer la destrucción de ese medio ambiente en el que se iba a situar hay que mirar a la margen izquierda os propongo ese ejercicio si alguna vez pasáis por allí desde la ona de la arboleda imaginaros

si le arrancáramos la piel de hormigón y de cemento que tiene por encima y digamos que la toponimia nos da una pista de lo que podía ser la margen izquierda hace ciento cincuenta años

el ecosistema efectivamente fue una de las víctimas del proceso salvaje de industrialización pero no la única evidentemente no sabemos si a víctor chavarri y al resto de patrones

les produjo la misma impresión que la destrucción medioambiental el comprobar las condiciones de vida de sus trabajadores y trabajadoras

de clasismo de lucha de clases de arriba y abajo

y de poblados mineros en la arboleda mientras unos vivían en pequeños ghetos burgueses con todo tipo de lujos y comodidades los trabajadores y trabajadoras de la margen izquierda se hacinaban muchas veces en condiciones inhumanas

de la zona minera por ejemplo que las heridas que allí presenciaban

en una fábrica que llegaba desde el cantábrico hasta el corazón de bilbao dicen que a las cinco de la mañana las calles eran un hervidero de trabajadores a tres turnos no paraba la producción

hay mucha historia que contar sobre la margen izquierda para muchos de nosotros es nuestra historia la de nuestras familias pero sería peligroso enfocar esta cuestión desde la lírica aunque da para ello da para la lírica da para épica y hasta para la epopeya si nos ponemos ya que se construyó toda una sociedad

se basó la prosperidad y la economía de todo un país pero no voy a hacer un panegírico sobre un mundo desaparecido sobre un mundo con muchos claroscuros

con pleno empleo sí pero con unos altísimos costes sociales en el cual

nos recordaba también al moloc del progreso

metrópolis o si queremos hacer un enfoque más jovial al chaplin atrapado en la rueda de producción en tiempos modernos

desde el modelo industrial a uno nuevo en el que cobraron protagonismo la construcción y los servicios

que ya hemos comprobado desgraciadamente que no estaba basado en un crecimiento estructural sano

en los principales parámetros socioeconómicos y en el fondo de este problema se hallaba lo que es una realidad innegable ezkerraldea había perdido su industria la llamada reconversión industrial

un eufemismo más decían reconversión en lugar de decir cierre como hoy dicen austeridad

o flexibilidad en vez de decir despido libre en realidad

en el que sobrevive un puñado de fábricas salvo excepciones de nivel tecnológico medio bajo

siempre con una espada de damocles pendiendo sobre su futuro bien sea por la situación económica internacional o por aspectos más sangrantes por inevitables como los costes energéticos

es el hospital de gurutzeta la segunda el ayuntamiento el estallido de la crisis ha dejado en evidencia la fragilidad del modelo de pueblos dormitorio y supermercados

y hoy se ha derrumbado como un castillo de naipes las alarmas llevan tiempo encendidas en esta comarca y los indicadores económicos han caído en picado ezkerraldea es líder hoy en día pobreza precariedad y desahucios algunos datos como la tasa de paro de sestao nos retrotraen a los años más duros de la crisis de los ochenta sestao un pueblo

a veintisiete mil en veinticinco años adibide gisa eta datua bonbardaketa ekiditeko

esaten duen moduan todo en ezkerraldea estaba diseñado

ha desaparecido los transportes las casas los pueblos el urbanismo

en base al cual se diseñó todo el eskualde provoca disfunciones graves hay mucha gente y poco empleo no ha habido recambio de modelo

diseñado para un modelo socioeconómico que hoy por hoy no existe y esas disfunciones se traducen en los alarmantes indicadores sociales que antes he mencionado esta es la realidad

y también de abandono por parte de las instituciones esto que es grave lo tenemos que decir también las instituciones de este país

no han sabido responder a las necesidades de este eskualde el viento de la historia se ha llevado las promesas de reindustrialización y ha dejado la cruda realidad de la desindustrialización

para algunos euskal herria se acababa en basurto no llegaba ni siquiera a zorroza el centro de gravedad de la economía vasca se ha desplazado de forma dramática dejando convertida a la margen izquierda en una zona periférica y esa condición amenaza con cronificarse

pasar de ser periférica a ser marginal ezkerraldea no ha estado y no está a día de hoy en la agenda de las instituciones vascas como la prioridad que debería ser

exigiría una atención institucional preferente aunque la historia fuera otra por la gravedad de sus indicadores económicos y su volumen de población recordemos que en ezkerraldea vive si incluimos la zona minera

de la población vasca pero partiendo además de nuestra historia esta atención institucional es una deuda moral una deuda histórica desde euskal herria bildu lo décimos con claridad euskal herria tiene una deuda histórica con la margen izquierda ezkerraldearen berpizte dinamikan barne zein kanpo indar guztiak

inplikazio aktiboa ezinbestekoa da partimos de la base de que el problema es estructural y ante ese problema estructural somos conscientes de que hacen falta soluciones estructurales económicas políticas y sociales y para dar respuestas estructurales necesitamos un planteamiento estratégico

propondremos entonces que la ponencia que va a constituir este parlamento avanzo evidentemente que ya hay una enmienda transaccional que cuenta

para salir adelante y por tanto este parlamento constituirá esta ponencia proponemos que esta ponencia afronte su actividad desde un enfoque holístico tanto en la dimensión temporal planteando medidas a corto medio y largo plazo

abarcando ámbitos como el urbanismo y el medioambiente transporte servicios pobreza empleo etcétera no se trata solo de ayudar a las empresas

la unión europea permite ofrecer ayudas públicas se trata de poner a la margen izquierda

y por el deterioro de su situación socioeconómica no se trata solo como decía de gestionar esas ayudas que ahora la unión europea permite dar aunque sea un punto importante que tiene que estar integrado en este trabajo se trata de integrar esas ayudas en un programa más amplio de reactivación

no digo evidentemente que este parlamento tenga una varita mágica ni que sea la única institución que tiene competencias o que tiene algo que decir

que lo que nos correspondería sería ayudar a dinamizar un debate que corresponde desarrollar a todos los agentes sociales económicos e institucionales implicados

se base en los parámetros del desarrollo endógeno tokiko garapena corregido en sus limitaciones cuando estas sean manifiestas es decir trataremos de buscar una estrategia

y que ayude desde fuera cuando estos recursos sean insuficientes con la reindustrialización como máximo objetivo en el horizonte y la búsqueda de sinergias

meatzaldea y enkarterri como referencia también queremos partir y queremos desarrollar un análisis completo

queremos conocer con precisión sus parámetros macroeconómicos y sociales su realidad hablar con sus representantes institucionales y con sus agentes sociales queremos saber también evidentemente qué nos proponen los que ya están trabajando en la zona porque evidentemente hay mucha gente que está trabajando con diferentes orientaciones pero que que hay que reconocer y del cual hay que partir pero queremos saber también en qué les podemos ayudar qué les podemos aportar tanto en un plano teórico como en un plano material con los recursos que desde esta cámara se puedan activar en este sentido y también queremos

compromisos morales y también compromisos prácticos legislativos y económicos hacia

hablar de la margen izquierda y de la zona minera de bizkaia es hablar

económico más intensos y masivos de euskadi en los tiempos contemporáneos pero todo ese impulso desapareció con el agotamiento de la minería y con la crisis y la correspondiente reconversión industrial de los ochenta

y con ellas toda la economía de la comarca la crisis produjo un importante paro estructural

y la aparición de ruinas industriales muy extensas que además de degradar la zona impedían un nuevo desarrollo urbanístico

que las instituciones concretamente los gobiernos central y vasco

y también los partidos políticos pnv partido socialista y partido popular

en mil novecientos noventa y siete ese plan acabó a finales del dos mil pero en enero de dos mil uno se firmó una nueva fase del programa de revitalización que incorporaba además de las actuaciones industriales de la primera fase

como las infraestructuras el empleo el bienestar social el medioambiente y la vivienda a esa fase se incorporó también eusko alkartasuna en definitiva ese plan con todos los problemas fue bueno porque ayudó a la comarca a salir de su postración

la margen izquierda y las comarcas aledañas también presentan hoy una situación peor que la media de euskadi en la mayoría de los sindicadores que se consideran clave

variación de la población envejecimiento empleo industrial pobreza cobertura de la renta de garantía de ingresos

por eso los principales esfuerzos de los últimos años se han focalizado en la puesta en valor de suelos industriales ociosos como consecuencia del cierre de empresas como altos hornos de bizkaia y los de la babcock para disponer de solares en los que pueda sentarse

empleo y riqueza aún así dos mil catorce se cerró

en paro en la comarca lo que supone un índice del dieciocho coma siete por ciento

además la margen izquierda tiene la mayor tasa de desempleo juvenil

así que no es solo la mala situación sino que también las oportunidades para las nuevas generaciones son menores

por ejemplo el índice de desempleo de los jóvenes es parecido al de la margen izquierda y la tasa global del quince coma uno por ciento a finales del dos mil catorce siempre más alto que la media de gipuzkoa oarsoaldea no está muy poblada son algo más de setenta y uno mil habitantes

es un espacio también socio económicamente deprimido siempre pendiente de una actuación estratégica

perdón la regeneración integral del entorno de la bahía de pasaia por eso la comisión europea ha declarado a estas dos comarcas oarsoaldea y la margen izquierda zonas desfavorecidas a los efectos de ser beneficiarias de ayudas para la reactivación

y este es un dato de mucho interés porque incluso la unión europea considera que estas dos comarcas necesitan ayuda específica para avanzar

y la creación de empleo se trata de revitalizar la zona dejada vacante

dotándola de infraestructuras modernas y ordenadas que permitan el asentamiento de nuevas empresas industriales terciarias

que potencien la creación de nuevos empleos pero se trata también de regeneración urbanística y de otras actuaciones que ahora comentaré es cierto que la situación en la margen izquierda y en oarsoaldea no es tan dramática como en la década de los ochenta

con distintas iniciativas pero aun así es imprescindible que trabajemos todos juntos para llevar a estas zonas a la situación socio económica promedio de euskadi sobre todo

por eso cuando en dos mil trece los socialistas acordamos con el pnv el plan para conseguir una euskadi más moderna solidaria sostenible y competitiva introdujimos medidas específicas para las comarcas con más tasas de desempleo unas ayudas

y de jóvenes sin experiencia laboral y otras para planes comarcales de empleo pero además de todas estas medidas de carácter inmediato la envergadura del problema

acción integral con el concurso de todos instituciones partidos políticos sindicatos agentes sociales agentes económicos industriales todos

un plan integral para años que desde una perspectiva global

eso no descarga al gobierno vasco de su responsabilidad de hacer todo lo que pueda con carácter inmediato

y se complementan la ponencia decidirá con el concurso de todas las instituciones y agentes que acudan cuales son las prioridades para lograr el desarrollo que pretendemos pero seguramente serán objetivos importantes en el empeño de conseguir un crecimiento sostenible para empezar una reindustrialización también

y para la que habrá que impulsar el uso de los suelos industriales ociosos especialmente de las instituciones y de las empresas públicas

disponemos de suelo magníficamente situado al lado de la autopista cerca del puerto pero ese impulso ha de ser para avanzar de una vez también en polígonos o parques empresariales como burceña o ibarzaharra que no acaban de ponerse en marcha habrá que abordar también una regeneración urbanística necesaria para un desarrollo de calidad no hay industria moderna en un entorno urbano

habrá que trabajar el medio ambiente la vivienda las infraestructuras de transporte y las de la comunicación habrá que ampliar y dar más frecuencia a las comunicaciones

al puerto con planes realistas que se ejecuten de una vez o para hacer ya

y junto a la reindustrialización y a la regeneración urbanística habrá que hacer lo necesario

las defunciones superan a los nacimientos y habrá que abordar el empleo y el bienestar social el impulso a los servicios también

el turismo cultural y podíamos seguir hay mucho por hacer hay que revertir la tendencia

un mayor equilibrio territorial y social y en todo ello será fundamental la colaboración público privada las instituciones deberían actuar también de palanca de la actividad privada que se prevea necesario en el plan

instaremos a las instituciones a ponerse de acuerdo y a poner los medios necesarios porque

a los índices de paro promedio de la comunidad y garantice un futuro sólido dada la situación solo pueden hacerlo las instituciones trabajando en común los ayuntamientos la diputación correspondiente y los gobiernos vasco y el central

para poner ideas para apoyar y para exigir hay precedentes que indican que esa es la solución sin ir más lejos así se hizo en el

y también en bilbao ría dos mil para terminar quiero enfatizar que creo que hoy no es un día

hoy nos toca arrimar el hombro porque es imprescindible revitalizar la margen izquierda

que hemos alcanzado quiero decir que todos los grupos entiendo favorables los firmantes y los no firmantes hemos considerado que ha sido

que la ponencia recoja las directrices básicas

mínimos para lograr estas cosas que he comentado sobre todo un futuro estable y sólido para la margen izquierda y para oarsoaldea no se trata de que el parlamento haga ningún plan

escuchar a todos los agentes que pueden tener algo que aportar establecer las directrices para que todos juntos trabajemos sacar adelante las dos zonas más desfavorecidas de euskadi no podemos permitir esa diferencia entre comarcas tan acusada en euskadi ni que

de los ciudadanos de euskadi gracias eskerrik asko reyes jauna

bien poco antes de comenzar el trámite para aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma vasca hoy en vigor el partido popular un año más planteaba al partido nacionalista vasco y al partido socialista

la necesidad y el ofrecimiento de consensuar un plan de reindustrialización para la margen izquierda y también nos brindábamos entonces

importante en todos estos municipios y también como partido responsable del gobierno de españa a implicar al gobierno central en este posible plan interinstitucional para el grupo popular este planteamiento fue clave en la negociación presupuestaria y presentamos una enmienda al proyecto de presupuesto por la cuantía de uno millón de euros

dinero que queríamos que se destinará específicamente para la reindustrialización de la margen izquierda

propuesta tan reciente y tan concreta pretendíamos compensar la falta de liderazgo e iniciativa

en mucha mayor medida con políticas concretas y con dinero también al gobierno vasco

pública a través de los medios de comunicación y lo que es más importante con una enmienda concreta en los presupuestos no fue respaldada por los grupos parlamentarios de esta cámara que acordaron y negociaron los presupuestos de dos mil quince

de euskadi no apoyaron la propuesta del partido popular de destinar un millón de euros para un plan interinstitucional de reindustrialización de la margen izquierda

hace unos meses sin embargo en febrero la consejera de desarrollo económico y competitividad arantza tapia anunció en un desayuno informativo en bilbao ayudas a la inversión industrial en zonas declaradas desfavorecidas por la unión europea se tratarían de ayudas a la inversión en margen izquierda y en oiartzualdea pero desconocemos su intensidad y también sus

hoy nos encontramos debatiendo una iniciativa de bildu que propone crear una ponencia en el seno del parlamento que estudie la situación de la comarca

al grupo popular esta iniciativa lógicamente no le puede parecer mal sobre todo la parte que propone interinstitucional de reactivación de la comarca más que nada porque es muy parecida a nuestra propuesta que no salió adelante en este parlamento

hoy no estaríamos debatiendo este punto y habríamos ganado tiempo y dinero

y por lo menos un millón de euros pero en cualquier caso nuestro grupo ha presentado una enmienda que no es incompatible con lo que plantea bildu pero que conociendo las intenciones ya declaradas del gobierno

le insta a que las materialice en definitiva que conozcamos cuánto dinero cómo y cuándo con nuestra enmienda queremos insisto que se concreten y se ejecuten que se materialicen las subvenciones

a ver si esta vez sí esta iniciativa viene a esta cámara en un momento está claro

de hecho un grupo de parlamentarios de bildu aprovechó su espacio de precampaña en e i te be ayer para vender su propuesta

pero insisto hoy vamos a

si de lo que se trata es de dar protagonismo y prestar atención a la margen izquierda pero lo que va a salir adelante es una ponencia y un compromiso de un plan a futuro y lo que hubiera salido adelante en su momento cuando el partido popular

un plan de reindustrialización hoy estaría vigente hoy tendría dinero y hoy tendría plazos los indicadores socioeconómicos son más que conocidos

sociedad vasca en las zonas a las que alude nuestra enmienda y lo que finalmente se aprobará

es todavía mucho más descarnada la atención a la margen izquierda y la necesidad de un plan de reindustrialización no es de ahora no es de precampaña al margen de lo que haga este parlamento que va a sacar adelante una ponencia pero que llevará

la que habrá mucho que trabajar la urgencia

y los ciudadanos tienen ahora una ocasión de oro para decidir qué propuestas municipales y forales pueden contribuir mejor a la necesaria reactivación económica de la zona porque hoy tendremos una ponencia en la que se trabajará

supuestamente tendremos un plan pero esta noche ya los candidatos se tienen que mojar y decir qué medidas en materia de impuestos

en materia de empleo tienen todos y cada uno de los candidatos a alcaldes alcaldesas y a diputados generales

el señor casanova ya ha adelantado la existencia de una enmienda transaccional

puesto que nuestra enmienda se ve reflejada en esa transacción

han expuesto someramente la historia de esta comarca y han aludido en el caso del partido socialista de euskadi al plan interinstitucional de finales

donde también intervino el gobierno del partido popular de entonces como estaría dispuesto a hacerlo ahora que ese fue nuestro ofrecimiento junto con la enmienda

si lo propusimos hace unos meses no veo ninguna razón por la que no debamos aprobarlo ahora y promoverlo ahora

y posteriormente se han introducido a través de las diversas enmiendas y en el propio debate de hoy

lo que nos alegra porque en ese sentido iba también nuestra enmienda de totalidad

es el municipio con mayor tasa de paro que en eibar también hay una gran preocupación por la pérdida de actividad industrial y que en zalla en estos últimos años

por ejemplo y que también han incidido en la situación de desempleo de muchas personas políticas por lo tanto de generación de actividad económica para todas las zonas de euskadi porque somos un país industrial y de servicios que debe seguir

sí es cierto que hay zonas que entran en lo que la unión europea ha determinado zonas que aplica la directriz de ayudas estatales de finalidad regional aunque para cada persona en particular la situación del desempleo es un quebranto de su proyecto de vida hay zonas de especial atención por los datos de desempleo que presenta

aurreko ekitaldiekin konparatzen dituena pero no nos parece importante solo fijarnos en esta foto o en el descenso notable del paro que acabamos de conocer referido

a nivel de euskadi de algo más del dos por ciento son fotos fijas

las diferentes formas el método de medición del paro sabemos que tenemos problemas profundos e históricos de desempleo en ciertas comarcas por lo que es importante fijarnos también en sus tendencias aunque en términos absolutos las cifras de paro de la comarca que engloba los municipios de barakaldo sestao portugalete santurtzi trápaga ortuella muskiz

su evolución ha sido la más positiva en el año dos mil catorce ya que el número de parados

lo que supone un tres coma uno por ciento menos que en diciembre del año dos mil trece el mayor descenso contabilizado en una comarca vizcaína el pasado ejercicio

ha sido una de las tres zonas de las doce comarcas en que divide lanbide el territorio de bizkaia en las que el paro subió el pasado años aunque fuese un mínimo

que la de oiartzualdea lleva muchos años siendo comprometida lo reconocemos pero una cosa

ha habido y hay ayuntamientos y gobiernos de diferentes colores políticos

y todos ellos aportando su granito de arena pero parece que la velocidad o las inversiones pues nunca han llegado a ser suficientes a lo que las diferentes comarcas demandaban

tampoco los condicionantes externos a la generación de actividad económica pura y dura o a la hora de atraer empresas a nuestro entorno han sido las más ideales

y por otro lado totalmente diferente creemos que también la actividad armada de eta tampoco es que aportara nada nuevo a la hora de atraer empresarios

en estas zonas y ha habido otros tantos factores adicionales que dejaré en el tintero pero que también han perjudicado en el progreso de las comarcas el gobierno vasco

está trabajando y está desarrollando el programa de ayudas para las zonas más desfavorecidas como

y el empleo por tanto hechos y no palabras apuestas decididas y mucho trabajo para conseguir noticias como la que tuvimos en el municipio de sestao ayer una empresa de itp que va a invertir

a doscientos personas de manera directa y no vamos a parar porque

es decir necesitamos seguir trabajando se pide una ponencia que analice la situación de la comarca

de margen izquierda ni por su grupo parlamentario por los que vayamos a desaprovechar ni una sola ocasión para poder hablar de las comarcas que lo necesitan pero la pregunta es hablar para qué

con qué objetivo qué podemos aportar que no se esté haciendo ya seguro que hay cosas cierto pero necesitamos duplicar el trabajo que ya ha hecho gobierno y ayuntamientos con empresarios y agentes sociales bueno pues no vamos a decir que no a la ponencia pero creemos que un importante trabajo ya se ha hecho por lo menos en la zona margen izquierda y zona minera

y de su situación socio económica como si no se estuviera haciendo nada por resolverlo no es así la comarca cuenta con una tasa de paro muy alta eso sí es cierto pero lo que más preocupa en la zona es la baja cualificación de las personas desempleadas dos de cada tres desempleados de la comarca no tiene ni formación profesional ni universitaria y las empresas

pero con una base de formación tecnológica podemos hacer una ponencia que lo trate no seremos nosotros vuelvo a repetir los que lo impidamos y que permita hablar en profundidad

pero mientras tanto el ayuntamiento de santurtzi y el de sestao han pactado la tercera edición de su programa prestalan en el que prevén formar

hay coordinación interinstitucional hay planes como el de reactivación de ezkerraldea que se concretó el pasado enero entre los ayuntamientos y diputación foral de bizkaia con ayudas y asesoramiento al emprendimiento

cuarenta promotores emprendedores para optar a montar su propia empresa por otro lado ayer mismo el alcalde socialista de portugalete presentó un plan de empleo sestao lo hizo

no es inalterable la situación del desempleo en margen izquierda por lo tanto una de nuestras últimas iniciativas han sido presentar dos programas en este caso en el municipio de sestao

a la convocatoria del fondo social europeo el objetivo activar a cuatrocientos personas desempleadas con una inversión de dos coma seis millónes de euros hay iniciativas en los ayuntamientos en la diputación

y lo digo con crudeza esperando que eh bildu proponga una nueva mesa de análisis en este caso a través de la creación de una ponencia en este parlamento

oiartzualdea aunque en la justificación que eh bildu hace

se trabaja se está trabajando en atraerempresas en formar a nuestras personas en presentar nuestra mejor cara en este caso como margen izquierda muy lejos de la que eh bildu

de su proposición no de ley reconozcan conmigo que margen izquierda es algo mucho más

y explotación laboral mesedez en margen izquierda hay muy buenas personas orgullosas de su pasado y sobre todo de su pasado laboral y de sus modestos o grandes pisos y de cómo han sacado adelante a las familias y desarrollado su proyecto de vida

sus hijas e hijos de aquellos que vinieron a buscar un trabajo o de aquellas que ya se encontraban aquí solo hablamos con mucho orgullo de la margen izquierda y les décimos a las empresas

buenos días señoras y señores consejeros y a las personas que han venido a escuchar este pleno lógicamente comparto la preocupación de los grupos parlamentarios por la situación en la que se encuentra tanto la margen izquierda como la comarca

como ya se ha dicho por parte de todos los grupos parlamentarios efectivamente las tasas de estas zonas en relación al paro son especialmente negativas y urge dar la vuelta

sin embargo no comparto que la vía para mejorar la situación de esas zonas sea la creación de una ponencia parlamentaria no creo que sea lo más eficaz en demasiadas ocasiones y ya tenemos algunas experiencias al respecto se crean ponencias parlamentarias que finalmente

ponencias hacen falta medidas concretas hechos en definitiva más que ponencias para discutir sobre lo que debe hacerse porque lo que debe hacerse básicamente ya sabemos lo que es para la resolución de los problemas de euskadi y en concreto los problemas de estas zonas los problemas que son específicos en algunos casos

de alcance por parte de todas las instituciones implicadas tanto las vascas como las de incluso el propio gobierno de españa derogar la reforma laboral acabar con la política de recortes impulsada por los diferentes gobiernos atender a los ciudadanos con menos recursos luchar contra la pobreza

importante impulsar medidas efectivas para crear empleo de calidad

abogar por inversiones productivas formar a las personas ayudar a las empresas y atraer nuevas empresas

y reactivar económicamente las zonas regenerarlas urbanísticamente y un larguísimo etcétera y también con medidas concretas específicas

algunas ya se han apuntado por los diferentes portavoces por lo tanto yo creo que lo que debe hacerse aproximadamente ya lo sabemos lo que hay que exigir en concreto son medidas

exigir a los gobiernos a los diferentes gobiernos la toma de esas decisiones o el cumplimiento de sus promesas en el fondo por lo tanto está todo inventado aunque no sea evidentemente fácil resolver todos estos problemas lo que se necesita en opinión de upyd más que ponencias parlamentarias que se alargan en el tiempo

y compromiso político decisiones políticas hechos medidas concretas y compromiso presupuestario es decir dinero en concreto

y destinar menos dinero a otras cosas que son mucho menos importantes sí me parece importante el punto cuatro de la transaccional que ustedes han firmado en concreto materializar las subvenciones a la inversión industrial productiva de las zonas declaradas desfavorecidas por la unión europea por parte vasco me parecía mejor la enmienda planteada por el partido nacionalista vasco que finalmente no saldrá adelante porque no contará con los apoyos

evidentemente se creará la ponencia parlamentaria y upyd participará

espero que sea útil para resolver los problemas existentes en esas zonas y obviamente para reducir también las desigualdades existentes en euskadi

probablemente cuando se hace esa acusación hay dos elementos por un lado que haya una buena propuesta encima de la mesa

pero en segundo lugar hace falta otro elemento y es que sea extemporánea y en ese caso no acepto por tanto la acusación

esta propuesta responde a un trabajo que se ha venido desarrollando por lo menos por parte de eh bildu en la margen izquierda durante meses un análisis extenso de la situación socioeconómica y una de cuyas conclusiones era que no había fuerzas endógenas en el eskualde para a la gravedad de la situación socioeconómica y que por tanto era necesario una implicación tanto de los agentes internos de la zona como de otros agentes institucionales externos una implicación

y también económico y por tanto a raíz de esa petición y de ese trabajo que viene de muchos meses atrás es cuando surge esta propuesta y si se ha traído ahora en estas fechas

que sea el día de hoy no estaba en nuestra mano que hubiera un pleno el día que empezara las elecciones

pero el calendario parlamentario es el que es pero sí que nos interesaba que fuera en estas fechas para que todo el mundo o por lo menos cerca de estas fechas para que todo el mundo se retratara

que es una propuesta buena para la margen izquierda no vamos a hacer una ponencia para hablar para hacer un informe más o menos bonito más o menos grande

y un instrumento además del que salgan compromisos concretos efectivamente que se materialicen en inversiones en compromisos y en políticas y por qué una ponencia efectivamente se están haciendo cosas todas las instituciones están haciendo cosas y también hay otros agentes sociales de la zona

pero esto es un trabajo que implica muchos ámbitos distintos que tienen que estar coordinados y que tienen que responder a unos objetivos comunes estamos hablando de que aquí

de intervención desde la unión europea hasta los ayuntamientos de la zona pasando por todas las instituciones

a una serie de guías o de parámetros que le den una dimensión estructural y estratégica no puede ser que cada institución

por su cuenta y no vale decir que se están haciendo planes de empleo porque los planes de empleo tanto los locales como la de la diputación son planes absolutamente insuficientes no hay una política

no tiene realmente ni una política industrial para el conjunto del país mucho menos la va a tener una política

para la margen izquierda y esta no es una ponencia que margine a nadie por supuesto que todos los parados en todos los lugares de euskal herria tienen derecho a prestaciones apoyo económico apoyo estructural para que se generen empleos que puedan ayudarles a salir de esa situación

las comarcas comunidades socioeconómicas con particularidades concretas

esa clasificación y utiliza ese instrumento de trabajo el eskualde y la comarca para nosotros es una realidad una realidad que los eskualdes las comarcas tienen una serie de parámetros en común que permiten afrontar su realidad

de esa unidad socioeconómica y que por tanto permiten y exigen que se desarrollen políticas específicas para cada uno de ellos y por supuesto que todos y todas

trabajen por generar solución a sus problemas de empleo pero evidentemente

y no hemos inventado nosotros el concepto de que esas zonas más desfavorecidas

una atención prioritaria por tanto no vamos a aceptar ni siquiera que se insinúe que el dar prioridad a la margen izquierda en el análisis y la proposición de medidas suponga ningún tipo de marginación o de exclusión de otras personas y ya decíamos que además si se llega a marcar alguna serie de criterios que pueda ser útil

pues evidentemente mantendremos y trasladaremos esas ideas o esos compromisos

hay que establecer prioridades y se suele empezar por lo que es más urgente y lo que es más urgente sin ningún género de dudas y a día de hoy es la situación económica socioeconómica de la margen izquierda

debería haber tenido un camino propio porque hoy y se está viendo en el debate

y nos hubiera gustado también que a través de otro proceso propio y con una relación y una participación también activa

pero en definitiva creemos que esta es una buena propuesta que es un instrumento de trabajo que no es un fin en sí mismo la creación de esta ponencia

para coordinar la acción interinstitucional y para proponer medidas que a día de hoy no existen de reflote y de relanzamiento estructural y global de toda la margen

sí yo brevemente para tratar de centrar de nuevo el tema

hacen cosas están haciendo cosas todas no creo que sea un día hoy para

están haciendo cosas el gobierno vasco el anterior y este

el partido nacionalista vasco con el partido socialista con el acuerdo que tenemos para promoción de empleo para reindustrialización

se están haciendo cosas en ayuntamientos ya que ha citado ayuntamientos como barakaldo con ayudas directas a empleo en portugalete con un plan de empleo

y es el sentido de la propuesta de hoy es que es tan gordo la situación es tan difícil que se necesita que todas las instituciones

sentadas en la misma mesa y con las directrices después de un análisis con los agentes de las zonas que marque el parlamento que aborde un plan

de la postración a esas comarcas sobre todo que las lleve a los sindicadores de bienestar de empleo promedio al menos para empezar de euskadi con el planteamiento en fin las reticencias que ha puesto sobre la mesa de que con el gobierno vasco bastaría o con lo que hacen los ayuntamientos

les parece a ustedes que bilbao ría dos mil ha sido algo bueno yo creo que sí

ha regenerado bilbao debería haber regenerado barakaldo y no vamos a entrar ahora en eso pero bilbao ría dos mil ha sido bueno por qué

pusieron terrenos unos esfuerzos voluntad todos para gestionar de acuerdo y llevar adelante las decisiones que tomaban y regenerar bilbao no se hubiera hecho solo si el ayuntamiento hubiera adoptado medidas para

o si el gobierno vasco hubiera solo dado ayudas para el desarrollo de bilbao o para el empleo en bilbao no se hubiera logrado

generosidad del gobierno de españa del gobierno vasco

es decir que para hacer empresas de envergadura en la que

impulsar o ejecutar y sobre todo poner los instrumentos los medios se necesita la participación de distintas instituciones entre otras cosas por lo que tienen los terrenos y por capacidad de gestión y capacidad de decisión para

lo mejor es que se sienten todos cuando la necesidad lo justifica y es el caso de estas comarcas para salir adelante luego yo les pido que

continúen una vez que han dado el apoyo hoy con ilusión en el trabajo que debemos hacer todos para sacar adelante a la margen izquierda

sí gracias presidenta bien la enmienda que finalmente va a salir adelante por unanimidad cuatro puntos el primero para constatar la grave situación algo que tampoco compromete en exceso a nadie el segundo y el tercero se refieren a la ponencia que insisto no creo que esté de más no era

en mi enmienda a la totalidad más que nada porque lo que vamos de

que este tema no pueda tener la importancia yel protagonismo que se les ha dedicado

en este parlamento que ha tenido ponencias con un abanico muy amplio y por tanto lo vamos a apoyar pero los trabajos de una ponencia por definición por su propio funcionamiento y procedimiento

un plan con las renovaciones institucionales de ahora con verano por medio entre una cosa y otra nos da dos mil dieciséis yo espero que la enmienda que volverá a presentar el partido popular en los presupuestos de dos mil dieciséis en esta ocasión se apoye porque

pero de los cuatro puntos de la enmienda quiero destacar el cuarto porque el cuarto y último punto para mi gusto que

de lo que se trata es de que se cumpla lo que anunció la consejera y eso se materialice en dinero y en plazos y además no está supeditado a los trabajos de la ponencia

del transcurso de los trabajos de esa ponencia esto se tiene que hacer porque se le insta ya no se le insta cuando finalice

de la ponencia y por terminar mi intervención decía el señor casanova que

pero es que para mí lo del electoralismo tampoco es nada malo al revés no voy a decir el tópico iba a decir la cursilería de que campaña es la fiesta de la democracia

ahí no te puedes escaquear en campaña hay que decir lo que vas a proponer y lo que vas a hacer y si encima aspiras a gobernar otra cosa es que creas que no vas a gobernar nunca entonces prometes el oro y el moro pero si quieres

y ahora los municipios de la margen izquierda y de oarsoaldea van a saber lo que los candidatos en materia de impuestos en materia de promoción de empleo en materia turística en muchos temas con lo cual ya digo que

sobre todo intentaremos conseguir dinero y compromisos para que se diseñen planes que inviertan en estas zonas pero ya digo que el electoralismo bienvenido sea porque ahora nos vamos a retratar todos con las medidas en esos municipios afectados y por último una pequeña mención a lo comentado por el señor reyes que

entiendo yo con lo que es el paradigma de colaboración interinstitucional que supone bilbao ría dos mil

conozco muy bien también dice con voluntad de todos con acuerdos con generosidad cierto es verdad que también la generosidad tiene porcentajes en esta sociedad y unos son

por cuota más generosos que otros otra cosa es la generosidad a la hora de tener protagonismo

y presentar a los ciudadanos las mejoras en el caso de bilbao o barakaldo etcétera

que tenemos por suerte en este país muchos referentes y muchos modelos de lo que es la colaboración institucional llevada a buen puerto y es lo que confío que si en el debate presupuestario en partido popular no tuvo

al resto de llevar adelante ese plan con esa inversión que ahora

cuando se terminen los trabajos de la ponencia esto se posible y en cualquier caso

a este plan haya terminado o no los trabajos de la ponencia gracias eskerrik asko

todas las instituciones son totalmente necesarias es necesaria la colaboración el trabajo interinstitucional y no dude

señor casanova en política hay dos maneras de actuar por un lado decir hablar y por otro lado hacer palabras o hechos y en este caso eh bildu en cuanto a la reactivación económica de las comarcas suele quedarse con la primera de las opciones es decir decir y hablar hoy nos propone una ponencia que abarque

y en otras comarcas y creemos que en vez de sumarse al trabajo que ya está en marcha en dichas comarcas pues lo que sus iniciativas proponen

reflexión y no hace falta solo reflexión sino acción en el año dos mil doce decía que también

planes de choque en este caso para enkarterri para la margen izquierda

en lo mismo que hoy unos antecedentes cuasi catastróficos para anunciar que se quieren reunir con todos los agentes para analizar la situación y le voy a leer muy brevemente lo que en aquel extracto del plan de choque para enkarterri decían porque lo tienen colgado de su propia página web

sin futuro para nuestros jóvenes y sin vida para nuestro comercio hostelería pero sí hay una alternativa y es la que presentamos eh bildu el uno de mayo que planteaba la necesidad del plan de choque
en el que uno de los isiltasuna mesedez subraya la necesidad de un debate

debate reflexión necesitamos acción necesitamos hechos señor casanova

no gobiernan pero esperemos y ojala algún día nos presenten en su hoja de servicios

en sus propuestas en materia de empleo así lo esperamos han tenido por otro lado también la oportunidad por ejemplo a través de la diputación foral de gipuzkoa para concretar sus propias soluciones las soluciones de eh bildu pues en gipuzkoa se ha estado cuatro años

con una profunda crisis económica que hemos estado atravesando cuándo eh bildu va a presentar hechos qué respuesta en positivo se ha dado desde eh bildu a conflictos como el de candy en bergara o la situación

hace unos días veíamos a la diputación de eh bildu retirar el proyecto que habían presentado para candy porque textualmente decía carece de la madurez

el plan garaituz de apoyo a las empresas guipuzcoanas en situación de vulnerabilidad que fue incluido en su hoja de ruta de gobierno para este año

con el grupo de eaj pnv de donostia

señores de eh bildu produce una inacción de gobierno

soluciones y termino ya porque ahí sí apoyo lo que la señora del partido popular ha dicho en su primera intervención que

una propuesta únicamente y exclusivamente en clave electoral aun así le reitero nuestra disposición a promover cuantas iniciativas hagan falta para que se pueda hablar más de la zona de margen izquierda de oiartzualdea no tenemos ningún problema

que necesiten un impulso por parte de las instituciones pero esta propuesta señor casanova no es sino electoral pura y dura reconózcamelo por lo menos

de buscar un acuerdo con este grupo hasta ayer a la tarde a las tres y diecisiete del mediodía en cambio sí le dio tiempo a usted a dar una rueda de prensa sobre el debate que hoy se iba a celebrar y por ello tenemos hoy también a representantes de su grupo

debate pero creemos que en cuanto a escenografía no han andado listos

y la implantación de un proyecto empresarial de alta tecnología en el polígono industrial sestao bai como conocerá la

filial del grupo itp y uno de los líderes europeos en el sector aeronáutico ha escogido concretamente el polígono industrial de sestao bai para instalar su nuevo centro de producción

para euskadi como no tanto por la inversión que va a realizar de veinte millónes de euros como por los doscientos puestos de trabajo directos que se van a crear esto ha sido gracias a la labor a la coordinación y al empeño que la diputación foral de bizkaia y el ayuntamiento de sestao han puesto y esto no se consigue todos los días se lo aseguro

de este proyecto hay mucho trabajo por detrás pero es que además son veinte millónes de euros y doscientos puestos de trabajo directos a los que

de sestao votaron no antes de ayer en el consejo de administración

ánimo porque tienen quince días por delante para explicar ese no a sus votantes

y queremos que este debate no lo protagonice exclusivamente este parlamento

de los colectivos implicados en resumen queremos hacerlo contando con opiniones expertas y con el objetivo del consenso porque los socialistas tenemos nuestra idea pero consideramos necesario contar con otras visiones sobre este servicio público

más allí de las coyunturas políticas concretas esto es lo que hoy queremos presentar a debate la reflexión que hoy trasladamos a esta cámara y al conjunto de la sociedad

como tantas de nuestras iniciativas parten del análisis de nuestra propia experiencia y del contraste con la sociedad desde que se crea e i te be hace treinta y tres años nadie hemos propiciado una reflexión integral sobre el ente pero es evidente que la no existencia de esa reflexión integral no ha sido porque no existan diferencias claras sobre el papel que debe jugar e i te be como servicio público de información debe afrontar los retos que existen en el mundo de la comunicación cuando los socialistas planteamos esta propuesta con un modelo base sobre el que trabajar en una comisión parlamentaria lo hacemos siendo conscientes de la historia de e i te be y de las respuestas que se han dado desde esta cámara han sido dos

en el año mil novecientos noventa y seis y en el mil novecientos noventa y ocho fueron hasta pioneras porque en euskadi fuimos los primeros en decidir que el director de la radio televisión

ajenas a los partidos dos reformas puntuales y junto a esas

ninguna de ellas global desde mil novecientos noventa y nueve hasta la pasada legislatura

hemos planteado modificaciones puntuales preocupados por diversos temas por ejemplo porque no se repitieran situaciones de interinidad en la dirección como la que se produjo en el caso del señor ortuzar también nos hemos preocupado por la sustitución del director en caso de fallecimiento o incapacidad por dotar de funciones y relevancia al defensor del oyente o telespectador por reforzar el contrato programa en resumen

debates puntuales que respondían a situaciones coyunturales en la gestión del ente he hecho un repaso de estas iniciativas y salvo error hay un hecho relevante en esta historia el partido nacionalista vasco

ni por las reformas puntuales la realidad es que al poco de iniciar su andadura en e i te be de detectó la necesidad

debía revisarse acorde con lo que se ha avanzaba en relación con medios audiovisuales y de hecho

hacerse quiero retomar del año mil novecientos noventa y dos las palabras de

porque creo que valen también veintitrés años después porque los socialistas las compartíamos entonces y las compartimos ahora

práctica del autogobierno y partiendo del concepto de servicio público esencial los medios de comunicación social de la comunidad autónoma del país vasco y en particular etb

para la información y participación política de los ciudadanos vascos así también como medio fundamental de cooperación con nuestro propio sistema educativo y de fomento y difusión de la cultura vasca teniendo muy presente y yo diría que especialmente presente el fomento y desarrollo del euskera

esto se decía en mil novecientos noventa y dos y sigue siendo perfectamente válido en dos mil quince porque siguen pendientes

financiado a través de los presupuestos generales debe entrar a competir con el resto de cadenas de cualquier manera y también el debate sobre cuál sería su posicionamiento en ese mercado cosas que no se han dado en realidad la crítica sobre la utilización control y monopolización ideológico política del ente por los responsables gubernamentales es mayoritaria

que han de implementarse para asegurar la independencia y pluralidad

por nuestra parte apoyamos decididamente mantener el servicio público una radio televisión no meramente comercial que fomente la cultura los valores humanos la convivencia en una sociedad desgarrada por la actividad terrorista nuestra opción en bien clara entre las cadenas comerciales y la bbc

también la bbc como modelo queremos que la e i te be se parezca lo más posible en un sentido global en cuanto a los informativos ya nos gustaría que los de etb se asemejaran a los que conocimos entre

en que televisión española en televisión española durante la dirección de fran llorente que coincidió con los gobierno socialistas de rodríguez zapatero

es que detectados los problemas no nos demoremos más tiempo en subsanarlos definiendo primero el modelo y realizando posteriormente las reformas legales pertinentes porque mientras la sociedad y el sector audiovisual ha avanzado vertiginosamente los últimos años

a las nuevas tecnologías con un éxito mediocre pues no se puede decir que esté dotado de la tecnología más avanzada se ha incorporado

se ha ampliado el número de horas de emisión por distintos canales el personal los costes

a una audiencia propia que de forma reiterada y tozuda elige de forma

el resto de las opciones televisivas tanto para informarse como para entretenerse los socialistas

creemos que son compartidos por la mayoría queremos una radio televisión pública que uno dé soporte al carácter de servicio público que le corresponde a e i te be incorporando previsiones relativas a la calidad

así como sus formas de evaluación y control dos que garantice su independencia política modificando el procedimiento de elección del director así como las competencias

cuatro que incorpore las modificaciones relacionadas con los cambios de carácter empresarial estructural y organizativo necesarios para la aplicación del nuevo modelo cinco se comprometa con la producción y difusión en euskara audiovisual vasca para favorecer tanto la rentabilidad del ente como el fortalecimiento

una e i te be moderna adaptada a las nuevas necesidades y a las nuevas demandas de los ciudadanos que recupere su carácter de servicio público y de reflejo de la pluralidad

y la oferta diferenciada que apueste por las capacidades de sus profesionales

más ágil y una dirección profesional que no pierda el sentido de lo público

pensamos que este no debe ser un estudio exclusivamente académico nosotros proponemos que las aportaciones académicas las unamos a las profesionales

los que hoy mandan en e i te be quieren que las cosas sigan igual que hasta ahora

la reflexión en manos de una dirección en quien esta cámara no confía según se ha demostrado reiteradamente

hacernos una pregunta queremos una radiotelevisión pública que todos los ciudadanos asuman como suya que apueste por la producción euskaldun de calidad

que apueste por contenidos exportables a otros formatos y territorios generando nuevos ingresos

traigamos a quienes saben y adoptemos la decisión política pertinente

es la que deberá decidir sobre el futuro de un servicio que hoy es cuestionado desde dentro por los propios profesionales y desde fuera porque son cada vez más los ciudadanos que se alejan del mismo

a fondo surja un modelo consensuado que trascienda las vicisitudes políticas que responda a los intereses de las gentes de euskadi y no a coyunturas políticas

hemos firmado una transacción con el grupo eh bildu que espero

por todos los grupos de esta cámara ya que en realidad lo que proponemos el fondo de esta enmienda transaccional es comenzar el debate integral

en estos treinta y tres años de e i te be queremos que ese debate se haga en el seno de una comisión especial siguiendo una metodología que la upv que aporte la universidad del país vasco pero lo sustancial lo fundamental de ello es que esa comisión se ponga en marcha ya

a partir del próximo periodo de sesiones de manera que antes

tengamos conclusiones haya un dictamen que sea el reflejo de todo ese debate de esos seis meses más o menos que vamos a tener para trabajar y que a partir de ahí

para que en esta legislatura se pueda comenzar con las reformas necesarias con las reformas que creemos importantes que creemos que son imprescindibles

de radio televisión público que todos los ciudadanos que todas las ciudadanas vascas necesitamos es un debate les proponemos a ustedes comenzarlo este análisis

esta revisión en profundidad integral de lo que es ha sido

muchas gracias señora presidenta señorías estamos de acuerdo con el grupo proponente

televisiones públicas realizaban en estos años reformas integrales revisaban su modelo la estructura su dimensión adaptación

nuevos retos tecnológicos de mercado las nuevas formas de consumo audiovisual exactamente en esos planteamientos que usted hace en la

proposición no de ley estamos de acuerdo con que mientras otras hacían su trabajo aquí e i te be no ha querido abordar más que con ajustes parciales parches esa necesidad

que en esta legislatura se ha detectado una enorme limitación por parte del

responder a los principios de objetividad de imparcialidad de legitimación de nuestro marco institucional y de nuestros marcos de convivencia de los valores democráticos e incluso de la promoción del euskera hemos tenido varios debates en relación con

en comisión en este mismo pleno se ha cuestionado y nosotros lo hemos hecho desde el grupo popular la propia gestión de recursos humanos en el ente público la gestión de personal la falta de control en las subcontrataciones y la negativa a abordar en serio

de la radio televisión pública vasca por eso es preciso a nuestro juicio es necesario repensar e i te be y desde ese punto de vista nosotros estamos de acuerdo en que

sobre su funcionamiento organización gestión los principios hablar también sobre los principios

el servicio público y sus objetivos sociales los controles públicos la participación la defensa del pluralismo la modernización de la casa la transparencia también hablar de financiación etc la dirección general

la dirección general del ente ha sido cuestionada por este propio parlamento hemos asistido a debates en los que efectivamente

ha quedado al descubierto la propia debilidad de la dirección su debilidad la pérdida de apoyos y desde luego creemos que es preciso seguir denunciando lo que nosotros entendemos que es una mala gestión del ente público

e i te be es sostenible desde nuestro punto de vista tal y como se está gestionando a día de hoy no es sostenible en el tiempo ni desde el punto de vista presupuestario

cumple lo que fija la ley con su servicio público

eso es cuestionable cumple con los objetivos de normalización del euskera desde nuestro punto de vista también deja mucho que desear en lo que tiene que ser uno de sus principios fundamentales en defensa

en nuestra comunidad no lo hace se dedica a otras cosas y desde luego e i te be e te be uno la que tiene el papel fundamental de la promoción del euskera desde luego no cumple a nuestro juicio con el papel que debería desarrollar en nuestra sociedad y una e te be uno con la que no se siente identificada una inmensa mayoría de nuestra sociedad en la que no se siente identificada concernida y desde luego creemos que no ha desarrollado

modernizado ni se ha actualizado a los tiempos para tratar de conectar

con capas más amplias de nuestra sociedad incluidos los jóvenes pues bien desde luego sí compartimos la necesidad de revisar de cambiar de mejorar y de redefinir lo que debe ser e i te be en los próximos años y por eso en nuestra enmienda tratábamos de

de manera inicial con esa comisión que nosotros desde luego defendemos la creación de una comisión especial para la revisión integral del ente público para la reforma integral del ente público e i te be y su adaptación a los nuevos tiempos y a los nuevos retos

otros modelos de referencia audiovisual

de referencia y de éxito en los que nos podemos

nos genera dudas el procedimiento que se plantea nos genera dudas el planteamiento

del parlamento vasco con la propia upv nos genera dudas este planteamiento de que sea la upv quien fije el camino

compartiendo los motivos que han traído aquí esta proposición no de ley y desde luego

también la colaboración de nuestro grupo a abrir ese debate

creemos que este planteamiento de la mano de bildu

con ese procedimiento a través de ese convenio de la upv que va a fijar la ruta el camino y la metodología

anunciar hoy una abstención a esa enmienda que han firmado tanto el grupo socialista como eh bildu en todo caso nosotros nos comprometemos a seguir aportando a ese debate porque creemos que muchas cosas todos tenemos que aportar la upv también

otros muchos tienen que poder ayudar a esta cámara y tiene que ser esta cámara la comisión

e i te be la que fije la ruta el camino y también la que abra el debate y pueda canalizar a través de la representación pública y la representación popular también la ruta hacia esa reforma integral de e i te be

el grupo socialista nos planteaba inicialmente la creación de una comisión especial para asentar las bases de la reforma de e i te be en la que además de los grupos parlamentarios

expertos y organizaciones sindicales dicha comisión

un dictamen con sus conclusiones en el mes de septiembre a fin de que antes de que acabe el año pudieran emprenderse las iniciativas de reforma que respondan a ese

del grupo socialista y también estábamos dispuestos a firmar una transaccional con este grupo pero finalmente el grupo socialista ha decidido pactar con eh bildu en fin espero que esto no signifique que comparte la e i te be que eh bildu defiende y plantea en todo caso nosotros habíamos planteado una enmienda para señalar

a alcanzar en esa comisión especial más allá de las aportaciones que cada grupo pudiera realizar dentro de esa comisión y nosotros hablábamos de la necesidad de impulsar una reforma en profundidad de e i te be

con el objetivo de conseguir que sea un servicio público realmente independiente y al servicio de toda la sociedad vasca y planteamos que esta comisión presentara sus conclusiones en el plazo máximo de seis meses por lo tanto comisión pero delimitando o señalando claramente cuáles son los objetivos a alcanzar que en nuestra opinión deben ser aproximadamente los siguientes redimensionamiento del ente

independiente del nacionalismo independiente del gobierno vasco independiente del partido nacionalista vasco dependiente del partido que gobierne independientemente de quién gobierne convertir a e i te be en un servicio público que atiende al conjunto de la sociedad no solamente a una parte de ella la nacionalista cómo ha ocurrido hasta ahora

que vienen de lejos y siguen muy vivos a día de hoy pero que se han mantenido en el tiempo el sectarismo de e i te be hoy día tenemos una radio televisión pública

para nacionalistas un ente que ha tenido y tiene como objetivo fundamental convertir a los ciudadanos vascos en nacionalistas vascos una radio televisión que ha trasladado una visión parcial

un ente que ha informado de forma profundamente sectaria y un ente que no ha respondido al interés general del conjunto de la sociedad la implantación de un mapa del tiempo nacionalista en los diferentes informativos de con ese objetivo de tratar de vendernos la gran euskal herria los informativos en general convertidos en monográficos

de la causa nacionalista el relato de los hechos ocurridos en navarra y en el sur de francia gota a gota día a día para vendernos ese proyecto nacionalista

la distribución de los tiempos entre los diferentes partidos políticos o entre las diferentes corrientes ideológicas que existen en euskadi dando siempre preeminencia y mayor relevancia al sentir nacionalista la temática sobre la que se insiste tanto en los informativos como en los debates insistentemente nacionalista temática preferentemente nacionalista temática prioritariamente nacionalista no solo los temas elegidos sino cómo se tratan esos temas

el lenguaje que se utiliza el modo de narrar lo que se cuenta los moderadores o muchos de los moderadores los presentadores o muchos de los presentadores las preguntas que se proponen por parte de los moderadores y los presentadores en las diferentes entrevistas o tertulias los comentarios que se realizan

de hechos que hemos venido denunciando en los últimos seis años en este parlamento para e i te be españa es un país extranjero y en demasiadas ocasiones el estado español

cuando se informa de lo que ocurre en el congreso de los diputados a los vascos solo nos representan o el partido nacionalista vasco o amaiur

según las mentes sectarias de e i te be los partidos vascos son los partidos nacionalistas

en fin qué decir de las víctimas del terrorismo habitualmente postergadas y maltratadas cuando deberían ser defendidas cuidadas y especialmente respetadas tenemos a día de hoy a una e i te be que ha sido incluso capaz de invitar

a un condenado por pertenencia a eta y por actividades terroristas por no hablar de los datos de audiencia que a pesar de que en una radio televisión pública no debería ser asunto esencial tampoco alcanzan los índices mínimos

al ente es decir que buena parte de la sociedad vasca ya decidió hace bastante tiempo dejar de ver y escuchar e i te be y esta es una realidad tenemos por tanto una

un ente nacionalista para los nacionalistas el grupo socialista presenta

el grupo socialista es corresponsable de la situación en la que hoy se encuentra e i te be por no haber impulsado cuando gobernó los profundos cambios que el ente ya entonces necesitaba el grupo socialista es corresponsable de la situación en la que hoy se encuentra e i te be por haber actuado con inmenso miedo y evidentes complejos cuando pudo actuar y no actuó

el grupo socialista es corresponsable de la situación actual de e i te be porque no hizo nada cuando pudo y no solo porque no hizo nada cuando pudo sino porque cuando upyd propuso

no solamente se negó sino que además legitimó con su discurso la situación que entonces padecíamos y hoy seguimos padeciendo el grupo socialista es corresponsable

e i te be y en concreto de que sea hoy día un instrumento sectario al servicio del nacionalismo vasco del pnv y del gobierno vasco el grupo socialista es corresponsable por haber acordado con el partido nacionalista vasco la elección de la actual dirección

por simples intereses partidistas a través de un pacto cuyo contenido real todavía desconocemos señores socialistas qué les ocurre tienen cargo de conciencia han hecho propósito de enmienda

o es porque tenemos elecciones a la vista qué saben ahora que antes no supieran por qué no impulsaron estos cambios cuando pudieron incluso cuando había mayoría para llevarlos a delante no vieron los problemas que ya tenía cuando ustedes gobernaron porque lo veíamos todos los demás salvo ustedes al parecer o fue que les falto audacia y valentía para impulsarlos

asumen ahora los planteamientos de upyd se han convertido en militantes de upyd

lleva años exigiendo lo que ahora parece exigir el grupo socialista si observamos no solo esta iniciativa sino la propuesta para debate que el partido socialista firmado por la señora media envió a los partidos políticos

y redimensionamiento de e i te be cambio en su línea editorial profesionalización y despolitización de su dirección más objetividad pluralidad veracidad

para plantear determinados cambios en e i te be es cierto hace dos años que defendimos aquí una iniciativa para modificar por ejemplo el procedimiento de elección

de modo semejante a como se hace en la bbc efectivamente aquí lo defendimos y el grupo socialista como todos los demás grupos votaron en contra una iniciativa que lo que pretendía era profesionalizar la dirección general despolitizar el consejo de administración de e i te be y proponíamos una fórmula y el grupo socialista dijo que no era necesario aplicar esa fórmula y resulta que ahora enarbola el modelo de la bbc por lo tanto ustedes votaron en contra en todo caso

integral de e i te be que tenemos que hacerla viable eficiente moderna y sostenible que tenemos que proceder a su redimensionamiento que tenemos que simplificar su estructura que tenemos que hacer que preste un verdadero servicio público de calidad

el conjunto de la sociedad vasca no solamente la parte nacionalista sino el conjunto de la sociedad tenemos que hacer que e i te be sea un medio de calidad profesional plural objetivo imparcial riguroso e independiente

y obviamente del gobierno de turno por ello además de reflexionar hay que tomar decisiones ya tenemos que pasar de las palabras a los hechos

para reformar íntegramente e i te be pero no compartimos el procedimiento que se plantea ahora a través de esa transaccional no lo vemos y tampoco se han

se propone ese procedimiento que era un procedimiento que planteaba inicialmente eh bildu pero que creo que el grupo socialista no ha explicado al resto de grupos por qué el cambio de postura y por qué ahora el procedimiento planteado por eh bildu

en fin yo creo que una cosa es buscar acuerdos para que la iniciativa propia salga adelante y otra asumir sin mayor explicación los postulados del grupo

no se han explicado por lo tanto sí a la reforma integral de e i te be no compartimos el procedimiento propuesto en esa transaccional gracias eskerrik asko maneiro jauna

el que originariamente presenta esta propuesta pensamos que está desarrollando en esta legislatura una oposición a e i te be absolutamente alocada oportunista con unas

y también con mucho electoralismo pensamos que

es de no sé si limpiarse alguna mala conciencia que debe tener o simplemente desestabilizar las instituciones y en este caso

me refiero y me referiré al documento que efectivamente hace unos meses el señor unzalu y la señora mendia presentaron públicamente resulta

no tiene música vasca no creo que está pegado a la realidad de e i te be ni a la realidad vasca pero en todo caso en todo caso

para modernizar e i te be y para hacer frente a los retos futuros que tiene es curiosamente semiprofesionalizar el consejo de administración muy curioso de modo que los socialistas la receta que proponen

introducir en el ente una serie de comisarios políticos con un buen sueldo sin nada importante que hacer si no es

el objetivo y el reto que tienen los socialistas de cara a e i te be es muy curioso pero eso lo único que produce es desestabilización

antes se lo decía el señor maneiro y yo también

por qué ahora es legítimo que nos hagamos esa pregunta por qué ese cambio por parte de los socialistas de postura porque están en la oposición y están haciendo electoralismo exactamente igual que con la convocatoria pública de empleo de eusko irratia exactamente igual

porque el señor surio en la anterior legislatura se hartó de comentarnos y estábamos de acuerdo en que nos encontrábamos ante la tormenta perfecta

y actuar prácticamente nada o al menos no en el modo en el que usted está en estos momentos aquí proponiendo

que en el pacto que tenían ustedes con el partido popular explícitamente se decía que iban a proceder a la reforma de la ley de e i te be por qué

y por qué ahora sí y entran estas prisas ustedes pretenden una reforma integral en tres meses puro

y actitudes que caen más bien en el campo de la

señor unzalu y eso que en la anterior legislatura

que lo que está actualmente estaba peor y sin embargo no hicieron nada bilduri dagokionez nik uste dut

nos impulsa una ley para promover el conocimiento y piensa que promoviendo una ley con una especie de varita mágica toda la sociedad se va a embarcar así directamente en la sociedad del conocimiento qué conocimiento cuando existen los niveles de fracaso escolar que existen

es una contradicción in terminis señor unzalu por una ley por cambiar la ley no pretenda usted

eskerrik asko bien yo no voy a entrar a dar demasiadas explicaciones de por qué traemos esta proposición lo hacemos porque lo consideramos oportuno y además lo he dicho en mi primera intervención la reflexión que hoy trasladamos a esta cámara parte del análisis de nuestra propia experiencia y del contraste con la sociedad es el momento que hemos considerado oportuno pero no es la primera iniciativa como ustedes saben

liderando en esta cámara todas las posturas que se están dando con respecto a e i te be

y si no vayan ustedes al diario de sesiones y vean quiénes hemos propuesto más iniciativas al respecto no es una cuestión electoralista no es una cuestión de hace

insistiendo en los problemas que tiene e i te be y lo que queremos hoy es no reproducir debates no volvernos atrás en los debates queremos abrir un nuevo campo

que partiendo de algo que yo creo que es mayoritario que he expresado aquí

como es la necesidad de una reflexión a fondo en e i te be hacerla de una vez ese es nuestro propósito eso es lo que les proponemos eso es lo que les preguntaba yo en mi primera intervención

queremos que todos los grupos que componemos este parlamento respondamos a la pregunta de si es oportuno debatir en profundidad sobre el modelo del ente de radio televisión pública vasca eso es lo que tenemos que respondernos

insisto reabriendo debates no estamos ni siquiera cerrando debates

pero queremos debatirla con todos ustedes y también con todos los agentes sociales que puedan aportarnos algo en este elemento que para nosotros es fundamental

y no reproducir debates y sobre todo no cerrarlos

un contexto en el que podamos expresarnos todos un contexto en el que se puedan verter todas las posiciones un contexto en el que podamos aprender de experiencias de la sociedad

hemos aceptado que la upv haga una primera consideración sobre cómo tiene que

y no por otra cosa hemos aceptado aquello porque lo fundamental es que queremos que se cree esta comisión especial para reflexionar sobre el modelo de e i te be pongámonos a trabajar no pongamos trabas a esta comisión sino pongámosla a trabajar aportemos allí cada uno nuestras posiciones y a partir de ahí como digo

de reflexión y tenemos todo lo que queda de legislatura después del primer trimestre de dos mil dieciséis

para implementar las medidas que sean necesarias para

un medio público como he dicho en mi primera intervención no tiene que ser para una coyuntura sino que tiene que tener una proyección en el tiempo muchísimo más amplia estratégica diría yo señor uribe etxebarria

que lo mismo hablan de integración de país que van repartiendo carnets de vascos por ahí

sí está haciendo electoralismo en este momento está usted en esa parte del péndulo de que nos da carnet de vasco a uno o sea nos quita a unos y se los da a otros no sé usted qué oído musical tiene para decir que

por parte de la secretaria general de mi partido y por mí mismo que no estaba hecha aquí

pero lo que usted no me va a decir qué es vasco y qué no es vasco a mí usted

esto está hecho desde nuestra reflexión la de los socialistas vascos y esto es nuestra aportación

que la pondremos sobre la mesa en el momento del debate pero insisto usted no nos va a dar ninguna lección de quién es vasco y quién no es vasco no nos va a quitar ningún carnet porque usted no los da

que esta cámara no debe debatir de nada que no le venga bien al pnv cuando al pnv no le viene bien es electoralismo cuando al pnv no le viene bien es

sacan ustedes cualquier argumento para qué para no debatir de aquello que ustedes no quieren que se debata

ustedes no han propuesto una sola iniciativa sobre e i te be nosotros varias y sobre todo en esta última legislatura pero también en las anteriores hemos propuesto varias reflexiones sobre e i te be pero claro ustedes insisto como no quieren debatir sobre e i te be

entonces ustedes lo que tratan es de atajarlo pero miren ustedes ustedes tienen veintisiete parlamentarios y ustedes no controlan esta cámara esta cámara va a decidir hoy que se abra esta comisión especial

ese debate en profundidad sobre e i te be se dé esta cámara va a decidir que esa reflexión que ustedes no quieren hacer para adaptar el medio de radio televisión público vasco a las necesidades actuales
y para que sea mucho más eficiente se a pesar de que a ustedes no les interese ese debate eskerrik asko unzalu jauna

yo básicamente bajo a la tribuna para dar la enhorabuena a los señores

y se han dado cuenta que efectivamente hay que reformar a fondo e integralmente

desde hace bastantes años y que ustedes no quisieron llevar a cabo cuando pudieron y cuando gobernaron y esto es importante que cuando uno gobierna y puede tomar decisiones aplique determinadas cosas para cambiar la realidad y efectivamente e i te be hay que cambiarla hay que proceder a una reforma integral de e i te be

gracias por defenderlo ahora y gracias por defender algunas cosas que hemos venido defendiendo nosotros prácticamente en solitario que hay que profesionalizar el consejo de administración

la dirección general que hay que convertir a e i te be en un ente

y que tiene que dejar de ser un instrumento al servicio del nacionalismo vasco del partido nacionalista vasco y del gobierno vasco efectivamente señor uribe

hay bastante consenso para afirmar que la actual e i te be está al servicio del partido nacionalista vasco y al servicio del gobierno vasco hay un consenso bastante amplio

ahí sí que hay consenso hay consenso también en la necesidad de reformar íntegramente e i te be

hay consenso también ahí hay también consenso en la necesidad de poner en marcha una comisión que impulse esas reformas hay consenso porque aunque parezca mentira hay consenso puede haber consenso aunque no esté dentro de ese consenso

para otras cuestiones no hay consenso efectivamente hay posiciones enfrentadas eh bildu piensa que e i te be tiene que ser un al servicio de la construcción nacional y por y para el euskera nosotros evidentemente no estamos de acuerdo en algunas cosas por lo tanto hay un acuerdo en otras muchas cosas no hay acuerdo pero lo que sí estamos de acuerdo e i te be está a su servicio en eso sí estamos de acuerdo

que usted diga que pretender profesionalizar la dirección general de e i te be es algo así como tratar de introducir en esa dirección general comisarios políticos comisarios políticos son ustedes los suyos es lo que se ha venido haciendo

una radio televisión que está al servicio del partido nacionalista vasco

la dirección general de e i te be como se ha hecho y se hace en otros países de nuestro entorno que tienen radios y televisiones públicas que funcionan bien y sirven realmente al conjunto de la sociedad y no solamente a una parte de ella

señores del partido nacionalista vasco asuman que ustedes están en minoría asuman que hay también vida inteligente aparte del partido nacionalista vasco

en muchas cuestiones y tratar de dialogar y acordar con el resto de los partidos políticos de esta cámara

a ustedes todo les parece electoralismo si se rechaza la ley de administración pública por una mayoría amplísima de esta cámara es electoralismo

un dictamen que a ustedes no les gusta es electoralismo si se trae aquí el debate sobre la reforma de la lth es electoralismo en fin reformar e i te be también es electoralismo yo les pido un mínimo de humildad el partido nacionalista vasco es un partido político bastante importante en euskadi sí es el que más votos recibe habitualmente sí es el que gobierna euskadi o desgobierna en este caso sí es el que está en el gobierno sí

hay vida inteligente más allá del partido nacionalista vasco hay vida inteligente más allá del partido nacionalista vasco por lo tanto asuman su realidad de hecho hay más vida inteligente fuera que dentro del partido nacionalista vasco pero en todo caso

y que en bastantes ocasiones el resto de la cámara la oposición pues tiene razón

que pretende impulsar y llevar a cabo por lo tanto humildad humildad asumir que están ustedes en minoría y reconocer que
el resto de partidos políticos de vez en cuando también acierta eskerrik asko maneiro jauna

por supuesto que más allá del pnv existe

pero me deberá reconocer que los más inteligentes están en el pnv si como usted bien ha dicho

la medida electoral en la medida en que somos el partido que mayor confianza recibe
en esta sociedad pues desde hace muchísimos años isiltasuna mesedez isiltasuna me admite

vale bueno yo creo que usted no ha leído señor maneiro la propuesta del partido socialista me da la impresión que no

que proponen del consejo de administración supone introducir comisarios políticos y es la propuesta estrella para modernizar e i te be y que para e i te be haga

sus retos futuros por parte del partido socialista con sueldos lógicamente es lo que existía en televisión española hasta hace poco y que el partido popular ha quitado bueno pues eso es lo que propone el partido socialista

de oportuno que considera usted señor unzalu al

porque yo creo que ahí hay un pequeño paso y consideramos que no es oportuno en estos momentos abordar un debate de esta magnitud dado el clima político existente y dado

enorme que están mostrando algunas fuerzas políticas teniendo en cuenta

pudieran existir en el mapa político y no me diga que nosotros como personas y como partidos políticos somos una especie de

que estamos absolutamente aislados de determinados contextos y le he intentado decir que me parece oportuno

y me parece de una actitud hipócrita y electoralista su actitud porque hasta hace poco estaban ustedes

adelante e i te be y el propio gobierno y no lo hicieron tenían instrumentos y además tenían la idea en el pacto que habían suscrito con el partido popular explícitamente decían que iban a reformar la ley de e i te be y por qué no lo hicieron

y otro tanto en lo referente a la convocatoria pública de empleo de eusko irratia ustedes han cambiado radicalmente

según están en el gobierno o en la oposición y eso no es mantener una postura coherente

en ustedes ni en su estabilidad política eso es lo que le quería decir en cuanto al consenso

consenso hay en muchísimas ocasiones nosotros evidentemente somos el partido mayoritario aunque estamos en minoría en este parlamento eso somos plenamente conscientes no se preocupen pero somos el partido mayoritario

no me negaran que el consenso se mide en función de si

siendo minoritarios y si la señora roncal me deja que la escuchó por ahí propia conversación

no estamos en contra de hacer una reflexión no estamos en contra de hacer una reflexión sino que nosotros lo que estamos es diciendo que existen instrumento en vigor

como es el plan estratégico y décimos e insistimos que por cambiar la ley no se va a cambiar la situación de e i te be así como si fuera una especie de varita mágica por tanto al debate sí